gracias señora presidenta para una vez que el partido nacionalista vasco nos iba

de españa es una pena que lo haya hecho fuera de tiempo le animaría que utilizara su segundo turno para que

línea de comunicación señor reyes

los problemas de comunicación que tiene usted con el gobierno vasco entre la falta de información que denuncia que le impide abordar este debate con más elementos de juicio y sobre todo impermeabilidad que usted manifiesta conociendo porque se ha hecho público los avances los movimientos y la disposición que hay para entenderse entre gobierno vasco y el gobierno de españa sinceramente no hace usted

una frase que he leído del último debate que tuvieron en este parlamento yo aún no era parlamentaria decía vamos a ver

útiles políticamente a los ciudadanos hoy aquí pues sinceramente creo que este debate no va a ser de gran utilidad y se lo podía haber ahorrado de momento y lo digo porque la iniciativa parlamentaria que se debate hoy es la reacción socialista

pastor pronunció en bilbao invitada por el correo en el marco del foro expectativas económicas la intervención de la señora pastor

ante un público numeroso y tuvo mucho eco mediático al fin y al cabo estamos hablando de un actor principal en las

inversiones que se están realizando en euskadi y esos reflejos que tuvo el grupo socialista para presentar una iniciativa en este parlamento no los han tenido ahora para con las nuevas declaraciones con la nueva situación

una de dos o haber retirado esta propuesta o haber hecho una nueva

y su iniciativa es extemporánea pero aún así usted se empeña en debatirla bien porque entre esa conferencia que dio lugar a esta iniciativa y este debate que estamos teniendo hoy

y el trabajo de la ministra en el país vasco y esta última visita que se ha producido el mes pasado lo que ha puesto de manifiesto es que se están sentando las bases para llegar a un gran consenso institucional en relación con el futuro de la variante subferroviaria

un acuerdo de una colaboración que pasa por un gran entendimiento institucional

y los ayuntamientos afectados sin olvidar también que se va a contar con las instituciones europeas

para esta conexión desde luego la proposición no de ley que presenta el partido socialista va en consonancia con las contradicciones que el partido socialista

reciente de las dos últimas décadas con respecto a esta infraestructura no voy a recordárselas yo ya lo han hecho

pero la iniciativa el tono de la misma

defendido desentona y mucho con la actitud del gobierno de españa

la señora oregi y con el consejo de administración del puerto de bilbao

que se da de plazo dos mil quince para concretar con el gobierno vasco el puerto bilbao y los municipios afectados el proyecto de la variante sur ferroviaria que servirá para sacar de forma rápida las mercancías que se cargan y descargan en los muelles del puerto no le parece señor reyes esto un buen punto de partida al partido socialista de euskadi desde luego la actitud y la disposición del ministerio de fomento

parece haberles dejado impertérritos como si el tiempo se hubiera detenido y no se estuvieran dando movimientos

manifestando otras actitudes y otros esfuerzos para llegar a soluciones que como todos han recordado aquí desde luego no son fáciles

no está finalizado al partido popular nos hubiera gustado que el partido socialista hubiera reaccionado no solo a las declaraciones que la ministra hizo en el foro de el correo sino también a estas últimas y se hubiera sumado a la voluntad de consenso y de cooperación que desde el gobierno de españa

desde luego las bondades y las ventajas de acometer una solución ferroviaria al transporte de mercancías son conocidas asumidas y compartidas creo que por todos

que la solución tiene que ser viable a un coste razonable que se pueda asumir y que resuelva los problemas del territorio solo así se entiende que aquí lo que se venga a trabajar es por un consenso y por una solución en cuanto a las

no compartimos y no la vamos a votar la

maneiro tampoco y como ya ha anunciado el señor zorrilla vamos a votar la enmienda del partido

la cuestión es evidente estamos en un año electoral hace un año se discutió en este parlamento este tema

no hizo nada respecto a la variante sur ferroviaria no ha hecho nada respecto a la solución del tráfico de mercancías

es decir no ha hecho nada la ministra ha venido y en noviembre ha dicho lo que yo he leído antes

han hablado el partido nacionalista vasco y el partido popular para sin tener nada en la mano porque aquí nadie ha presentado nada y lo que ha dicho la señora ruiz

la representante del partido popular es que durante dos mil quince se hará una propuesta yo no he oído a ningún representante del gobierno vasco bueno el gobierno vasco no ha hablado conmigo claro

pero no he oído a ningún parlamentario hoy al señor zorrilla yo no le he oído decir

aunque sea de intenciones dónde está porque basta con venir aquí y enseñarlo y lo hemos terminado hay mediático porque se acercan las elecciones y luego dios dirá pero hombre de aquí a mayo estamos moviendo que hay una solución para los vecinos de ortuella de trapagarán y lo demás ya se verá que sí que son intenciones que como el partido socialista no hace caso a intenciones después de años colaborando con la gente en plataformas en la calle dando la cara después de que

de que había que dar una solución que no pasara por los núcleos urbanos después de que el año pasado hice lo mismo que estoy haciendo hoy fíjense tratar de evitar un perjuicio para los ciudadanos de la zona minera una de las zonas más castigadas de euskadi también

que atraviesa como venas podridas los pueblos de la zona minera que impide la regeneración urbanística y que impide calidad de vida y ustedes están diciendo que van a abrir el túnel de serantes sin dar una solución porque solución aquí

dónde está el convenio de intenciones no hay ninguna solución

a mercancías el puerto de bilbao es verdad lo dije yo hace un año es el que tiene mayor tráfico del arco atlántico

aumentará el paso de mercancías y lograremos quitar camiones de la carretera es cierto

y resulta que la propuesta aprobada del partido nacionalista vasco tiene dos párrafos en los que solo habla de la variante sur ferroviaria cómo puede venir a decir ahora que está haciendo la variante sur cuando los trazados actuales que dicen proponer

si la variante sur acuñada para toda la población es el trazado que libra el gran bilbao que va más allá de basauri que con la y vasca que da salida a toda la mercancía

dónde está la variante sur están haciendo una trapacería están haciendo

aplaque a la gente mensajes sin contenido y con mentiras

no es la variante sur dígame usted dónde estaba en el trazado de la variante sur lo que hoy ha dicho que propone

respecto y me importa a la petición de información a la consejera

yo lo hice limpiamente una llamada telefónica y le dije que de verdad era para aclararme para que me dijera un poco cómo estaban las cosas podía haberme dicho que no tenía nada concreto y que no tenía nada que decirme pero me dijo textualmente y lo digo porque le ha mentido a ustedes y ya lo siento que están trabajando con fomento no hay nada concreto y que

y que me daría una información hasta hoy y esa es la verdad no es cuestión de que haya pedido una solicitud de información documentada o no si me hubiera dicho que no es que no

de eso estamos hablando de falta la información consciente después de haber dicho

entonces señora

una transacción a otro grupo ese grupo habitualmente y usted está curtida da una alternativa

o hiciera o compusiera la figura para hacer una transacción yo le ofrecí una transacción y no hubo más ahí se acabó la cosa lo puede entender porque son posturas muy alejadas

cuando salgamos de aquí todo el mundo tendrá que retratarse en el valle tendrá que retratarse en ortuella todo el mundo tendrá que hacer eso

eskerrik asko intentaré compensar el tiempo de antes he decirle he de reconocerle a usted
señor reyes que tiene mucho atrevimiento yo diría que un atrevimiento superlativo rayando

como le decía también el señor damborenea en la comisión de diciembre usted tiene la costumbre de pedir que otros hagan

no he oído ninguna respuesta los datos le he facilitado el nueve de abril de dos mil trece no creo que fuera año electoral ya este gobierno se puso en contacto con el ministerio de fomento

otros datos fíjese que fácil lo tenían ustedes para no perjudicar a los vecinos de ortuella y trapagarán y facilitar el levantamiento de las vías de santurtzi durante los años dos mil nueve a dos mil once coincidían los gobiernos socialistas de gasteiz y en madrid fíjese señor reyes en tres años si hubiesen querido cuánto se podría haber avanzado en este tema pájaros y flores como suele decir usted señor reyes

como por ejemplo el intento de extender el metro hasta castro urdiales a pesar de que el mandato parlamentario le decía el lehendakari lópez que priorizase la variante sur ferroviaria tuvieron ocasión lo tuvieron en un cajón en el dos mil ocho lo metieron en un cajón y ahora vienen a que otros resuelvan los problemas claro que es año electoral usted lo decía y que pretende hacer

el gobierno está trabajando en colaboración con el ministerio y están trabajando

desde el dos mil nueve al dos mil once quizás es por eso porque se acercan las elecciones y están tratando de recuperar una zona que perdieron

pero por otro lado por sus incumplimientos en la zona y por ende por su falta de credibilidad

nosotros también pero ustedes haciendo qué nada nosotros

y por eso apostamos por ella y una cosa le solicitaríamos que no genere más alarma e intranquilidad a los vecinos y vecinas de la zona y que deje hacer que el planteamiento en el que está trabajando el gobierno vasco con el ministerio de fomento

trapagarán y santurtzi además de mejorar y garantizar el tráfico ferroportuario es más le animamos a usted y a su grupo a apoyar nuestra enmienda de totalidad

ya le hemos dicho que no nos sorprende en absoluto su posición estamos en el no en la comisión decía literalmente gu ezezkoan gaude a ver si empiezan a superarlo y se van pasando al tal vez para llegar finalmente al positivo

indirectamente o directamente al túnel del serantes a la variante sur ferroviaria al tren de alta velocidad

en el tiempo o retroceder a otro siglo donde sus planteamientos probablemente sean más ecológicos no lo discutimos

pero cada vez más pobres con menos actividad económica productiva con más desempleo y por tanto con menos ingresos para el desarrollo de las políticas sociales y nos tendremos que dedicar

para este sector tan importante en nuestro país los datos de producción de impacto económico del puerto de bilbao que antes no los he facilitado genera setecientos millónes de euros

bruto del país vasco y generan cerca de diez mil puestos de trabajo directos

como en este caso en el año anterior quinientos cincuenta millónes más para políticas de empleo para generar empleo y

finalmente el pp ahora sí dentro del tiempo justo

un pleno sí y otro también ello sería buena señal para los intereses de euskadi eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna

gracias presidenta señor zorrilla les cuesta pocos segundos pero en fin siga intentándolo

el señor reyes que la cuestión es evidente es año electoral y claro gobernar

se convierte en una campaña permanente pero no es que

quizá conozca las teorías de blumen tal día por los años ochenta del siglo pasado más actuales en este siglo de morris que hablaban de eso es que gobernar es una campaña permanente

tomando decisiones sí es año electoral para mí para usted y para todos también lo fue el año pasado también lo será el siguiente es que estamos

implica tomar decisiones gobernar facilitar acuerdos y buscar soluciones

un convenio de intenciones usted sí usted puede llamar informalmente a la consejera y dejarse de formalismo de petición de información documentada pero a los demás nos tiene que exigir un convenio de intenciones no le vale la palabra de vasco

pero bueno en su ánimo no está conseguir consensos yo creo que usted hoy ha quedado en evidencia y está dando para hacer campaña electoral que no decisiones de gobierno para algunos municipios concretos de cara a las municipales nos ha acusado de aplacar a la gente querer aplacarla dándoles balones de oxígeno de mentir de electoralistas

mimbres difícilmente veo yo que se puedan sumar a ningún acuerdo en este año que como es electoral y tenemos elecciones en mayo

pues entonces no creo que contemos con ustedes para remar y buscar una solución

para hacer del puerto algo más competitivo en definitiva todos le han recordado lo que ustedes pudieron hacer y no hicieron mientras gobernaron y es que

siquiera de lo que pudo haber sido y no fue eso sí exigencias

mire por suerte nuestra responsabilidad es gobernar

y usted tiene la capacidad de controlar al gobierno aquí y también en el congreso de los diputados y va a poder comprobar

lo que ha sido una disposición de intenciones aunque no esté reflejado en un convenio se va a ir traduciendo
en realidades y si no al tiempo gracias eskerrik asko ruiz andrea eztabaida amaituta bototara

gracias señora presidenta señorías señor lehendakari señora consejera

el sector ovino es el gran olvidado por el gobierno vasco

si nos fijamos en el diario de sesiones de esta cámara periódicamente aparecen iniciativas referidas al sector ovino que hacen mención principalmente a problemas problemas en la recogida de leche problemas de impago problemas de fraude en algún momento que fue sancionado pero que puso a la denominación de origen

en una situación límite hablamos de comportamientos irresponsables y en algún caso como les decía ilegal de determinadas

la empresa aldanondo se lleva la palma en estos comportamientos empresa aldanondo cuyo padre y madre es el gobierno vasco

eran pocos los pastores que se dedicaban a esta producción y esta empresa ayudaba a generar volumen para poder tomar una posición en el mercado

el gobierno le alimentaba muy bien y atendía sus caprichos y de repente el niño se convirtió en un monstruo caprichoso

y sus comportamientos han sido despreciativos para los pastores e incluso ilegales como les decía en algún caso la empresa

que el volumen de producción es muy bajo que para ellos los costes son muy elevados

porque las ventas habían caído el consumo se había reducido por lo tanto no tenía porque recoger la leche

el gobierno hizo un esfuerzo para intentar agrupar a productores y generar un volumen más elevado de recogida y ganar capacidad de producción para tener más capacidad de negociación

febrero de dos mil quince tres campañas estamos en la cuarta esta empresa debe

que le han entregado la leche una importante cantidad de dinero hablamos de seiscientos mil euros que son a pequeños productores tres campañas ya anteriormente había habido retrasos

insoportable si la cifra es importante para cada uno que ustedes me dirán algunos no han cerrado por qué porque no es la única actividad porque con esto no pueden vivir y tienen otras actividades complementarias pero sí que como les decía la cifra es importante el daño que hacen

porque es imprescindible para mantener el paisaje para mantener la ordenación del territorio para mantener la cultura las tradiciones para mantener una elaboración tradicional con arraigo en nuestra comunidad autónoma y también reconocida fuera de ella y con ganas de salir también al exterior aunque al gobierno no le parezca muy bien

el daño es importantísimo los dos años que lleva este gobierno de legislatura esta circunstancia se estaba dando ya

preguntamos al gobierno qué estaba haciendo para solucionar esta cuestión bueno

le dio un dinero a aldanondo para que pague a los pastores y qué hizo aldanondo pagó a algunos a algunos que pertenecen a un síndicato con el ánimo de que no hablen de callarles la boca y al resto que no estaban síndicados o que no eran tan relevantes

esta es la práctica de aldanondo la consejera nos dijo en esta cámara que efectivamente estaban buscando otra empresa

y de la deuda que tiene con los ganaderos pero es que aldanondo además arrastra otra deuda en el año dos mil seis

aldanondo decidió hacer una estructura nueva pidió

las ayudas que les podía corresponder al gobierno vasco tuvo las ayudas coincidió en los meses paralelos que se les pagaban las ayudas cuando

pero al parecer que ya se preguntó entonces el gobierno

y además pidió unos créditos reintegrables que no ha devuelto que ya tenía que haber empezado a devolver de los cuales solo ha devuelto

para las arcas del gobierno vasco y un fiasco para el sector ovino y un fiasco para la comunidad autónoma vasca porque el sector ovino

importantísimo por todo lo que les he dicho porque es una actividad económica en el ámbito rural y porque genera unos beneficios

el territorio la cultura las tradiciones como les decía muy importante en el sector primario como les decía

algunas explotaciones síguen manteniéndose pero ustedes se imaginan un joven que conoce esto

cree que tiene ganas que ve futuro qué puede tomar esa decisión este panorama desde luego ha incentivado a que muchos jóvenes no tomen esa decisión y esto también perjudica en lo que es la renovación generacional del sector que tan importante es por lo tanto señorías

nosotros lo que presentamos en su día porque entendíamos que estábamos en una sítuación límite es que el gobierno

que le devuelva que dé a los ganaderos

encuentre esa empresa que supuestamente estaban trabajando y que parece que ya está

esa empresa incorporase ese dinero al gobierno vasco al fondo que se creó en su día creo que sería adelanto como un anticipo para solucionar esta cuestión tan importante como es

la iniciativa que nosotros presentamos era efectivamente que el gobierno crease ese fondo y luego lo que decíamos que ahora está en periodo de negociación las líneas

que en las líneas de ayuda se fortalezcan aquellas que inciden de manera favorable para el sector ganadero y especialmente para el sector de ovino y nos referíamos a las ayudas y las líneas

el rejuvenecimiento del sector y también ayudas que

de jóvenes y ayudas que fortalezcan al sector productor a sus estructuras porque es importante los grupos presentaron enmiendas

y como también hemos tenido conocimiento porque esta iniciativa se presentó en octubre y la estamos tratando en febrero que parece ser que hay una empresa que se va a hacer cargo

en la enmienda de transacción lo que décimos es que el gobierno vasco utilice todos los medios jurídicos y administrativos a su alcance para que aldanondo

la deuda que tiene contraída con los productores de leche así como facilitar e impulsar las relaciones comerciales de los afectados con otras queserías

y medianas queserías y realice un mayor control de las ayudas que destina que realice el trabajo interinstitucional y sectorial para estructurar y vertebrar la producción de leche de oveja latxa en

de latxa esnea y otras que pudieran crearse y la pequeña y mediana transformación como por ejemplo

que haga el trabajo por el que tiene competencia y en el que tiene ayuda a vertebrar el de la producción de leche de oveja y la transformación además le décimos que ejerza la presión administrativa para organizar el cumplimiento de los compromisos contractuales entre productores de leche y compradores teniendo en cuenta que los productos perecederos

es que cumpla la ley de control de la cadena alimentaria que creo que es muy explícita y que marca el ejercicio de la labor que desde la administración hay que hacer para controlar que no haya abusos en los procesos que se dan en la cadena alimentaria

los abusos que se hacen en determinadas ofertas en algunas superficies etcétera etcétera etcétera y también décimos que de acuerdo con las diputaciones forales

refuerce las medidas de apoyo específico a las producciones

generacional es la enmienda que hemos firmado los tres grupos yo espero que el grupo nacionalista vasco que no entiendo porqué no ha firmado esta iniciativa lo apoye al final porque creo que es muy importante lo que en ella se dice

han ikusten da aldanondo eta comprometidos con nuestra tierra leloa

gracias presidenta buenos días señorías hay ayudas a los productores y hay ayudas a algunas empresas productoras hay ganadería que ordeña su ganado todas las madrugadas y hay un gobierno que no les hace llegar

hay productores que intentan mantener un modelo productivo de desarrollo rural sostenible y un gobierno que dice ayudarles pero que destina los recursos donde no deben y que no hace cumplir la ley sobre los pagos debidos

eso es lo que nos ha traído aquí y hoy quienes creemos que son los productores quienes ordeñan sus ovejas cada mañana lo que luego hace el queso

que a nosotros nos prestigia quien debe ser ayudados en un esfuerzo somos los que pedimos girar la mirada hacia los pequeños y medianos productores

el sector ovino en la comunidad autónoma vasca está atravesando un momento difícil y de asfixia

derivada de la falta de valoración de la actividad agrícola y ganadera de la situación económica y estructural que está sufriendo de la reducción de ingresos de sus productos y que se han disparado a causa del repunte de los cereales de los combustibles

cada vez más fuerte que obliga a la operación del sector a incrementar su competitividad pero también todo

las disminuciones de las ayudas públicas todo afecta y lo que hace grave la situación de los productos son

no son rentables subidas incontroladas de los productos de explotación

piensos para los ganados abandono de las explotaciones por su escaso rendimiento incertidumbres sobre el futuro de la política agraria común

las explotaciones ovinas han tenido y tienen que realizar una importante inversión para mejorar sus instalaciones ganaderas renovando

no es solo una forma de ganarse la vida es un modelo de producción y un modelo de vida a pesar de su modesta rentabilidad

y modelo de producción tiene un problema en origen muchos pastores en gran parte ya mayores entregan su leche de oveja lacha a una empresa de larga tradición en el panorama agroalimentario

y que llevan muchos años de ellos sin percibir cantidad alguna por la leche entregada estos pastores se encuentran entre la espada y la pared pues alimentan sus rebaños con una alimentación muy cara

sin que sepan si van a cobrar o no y en el mejor de los casos cuando lo hacen

otros los más afortunados han entregado su leche a otras queserías y siguen dentro del sector no daré el nombre

los socialistas no queremos perjudicar una producción de mercado que quiere atender a las necesidades de quienes le permiten tener mercados

en la apertura de mercados para el queso idiazabal ahora bien

no justifica las últimas actuaciones de esta empresa el sector del ovino de leche pasa por una situación crítica

el productor que hace posible esa comercialización entrega su leche pero son muchos

que está sufriendo el sector una cifra difícil de cuantificar porque muchos ganaderos no se atreven a denunciar

con lo que esto supone para muchos productores de leche junto a esta denuncia

los datos del sector de cuatrocientos veintisiete caseríos que se dedicaban a la venta de leche para la denominación de origen idiazabal hemos pasado a la mitad doscientos cuarenta y uno

la empresa que no quiero citar porque afecta a una marca y afecta a los productores ha recibido ayudas del gobierno vasco por un importe
de cuatro millónes doscientos sesenta y seis mil seiscientos treinta y tres euros isiltasuna

de un anticipo reintegrable de tres millónes de euros y de los cuales la empresa solo ha devuelto noventa mil euros las ayudas destinadas al sector

no van al sector van a una empresa desde el partido socialista

que destina sobre todo cuandoquienes deben ser apoyados por las ayudas que son los ganaderos

los que hacen posible que esta empresa exista sufren impagos que en muchos casos han obligado al cese de la actividad en la que trabajan

condena a la desesperación de las pequeñas y medianas queserías que a día de hoy serían una ayuda para el futuro del sector productor este gobierno debe realizar y pedimos que así lo haga un cambio de políticas para impulsar a la pequeñay empresa

empresas que deben ser el futuro del sector productivo pedimos que se cumpla la ley quince barra dos mil diez que establece que los pagos de los productos frescos y perecederos

en el plazo de treinta días y que se endurezcan

en caso de impagos nos parece necesario una reestructuración del sector ovino de leche y unas políticas públicas que tengan en cuenta

con denominación de origen idiazabal pero si la situación actual continua qué pasará con esos productos en diez años

pastores van a quedar en estos diez años esa es la pregunta que todos nosotros debemos hacer qué queremos hacer cómo les queremos ayudar

debemos trabajar en la potenciación de los contratos agroalimentarios para garantizar los precios las explotaciones y la calidad de los productos debemos realizar un plan para la mejora del sector ovino para responder a las demandas de calidad

debe existir un diseño junto con el sector ganadero de una estrategia específica fundamentada en una cadena de valores que incluya las explotaciones viables el acuerdo al que hemos llegado recoge las inquietudes preocupaciones

la petición que recogen necesaria para cambiar el rumbo y realizar un cambio de políticas

para evitar su desaparición empresas que deben ser el futuro del sector productivo nos parece fundamental la coordinación y todos los acuerdos que se puedan llevar a cabo para trabajar conjuntamente con las diputaciones forales y dentro

legebiltzarkideok egun on berriro guztioi ante el error de la llamada votación y por tanto la inesperada entrada de más público espero aburrir menos que las ovejas pero el tema viene difícil para

con pequeñas oscilaciones anuales y más

contribuye con un treinta y dos por ciento a la producción final agraria y el sector ovino de leche

es un veintidós por ciento del total ganadero pero es de enorme importancia como ya se ha dicho aquí por la aportación que hace a la gestión del territorio conservación de paisaje a través del pastoreo

creo que merece la pena intentar enmarcar el sector en el agro vasco si en dos mil dos

en cinco mil doscientos explotaciones con una media de cincuenta y siete ovejas

y una producción de leche de diez coma tres millónes de litros en el dos mil doce fue de doscientos veinte mil cabezas

con una media de treinta y ocho ovejas y un total de siete coma cuatro millónes de litros es decir en diez años

y la producción de leche no obstante y considerando que la producción más valiosa es la de queso

aunque entre medias había tenido un pico mayor es decir tenemos un incremento de explotaciones en el tramo de lo que se llama ovejas jardineras de menos de veinticinco cabezas

es decir el sector se ha empequeñecido en las explotaciones todo ello

deba una importante cantidad de dinero a un importante grupo de pastores se pone en riesgo esos pastores lo que en sí mismo no significa que el sector esté en riesgo es decir siendo un problema importante

aunque pueda ser el más urgente especialmente para los pastores que todavía no han cobrado contra lo que pueda parecer por la proposición presentada

y especialmente sobre el problema específico de los impagos otra cosa es que la propuesta inicial de la señora lópez de ocariz era inviable

porque supone volver a la senda de lo razonable

es simplemente constatar una realidad que resultó y resulta enormemente difícil de solventar en tanto se trata de una empresa que estructura parte del sector parte no todo el sector

mantenerla con otro modelo de gestor y gestión y no gastar más dinero público si no es para un plan de viabilidad creíble con nuevos gestores y gestiones

de difícil solución pero tampoco duden que el gobierno está trabajando intensamente en el tema pues bien tratado este asunto

y con alternativas de suministro para los pastores víctimas de los impagos

y profundizar en un sector que como ya he dicho es de vital importancia para el mantenimiento del espacio del paisaje y del mundo rural y que a logrado producir transformar y comercializar un producto que se identifica con nosotros con nuestro país con nuestro mundo rural

se ha venido elaborando y está a punto de terminar un plan estratégico que están haciendo conjuntamente el gobierno vasco el gobierno navarro con la participación intensa del sector del grande del mediano del pequeño y del chiquitín de todos

insuficiente para mantener una marca y garantizar una estabilidad futura debería favorecerse el incremento de queserías tanto artesanales de pequeño tamaño como algunas de mayor capacidad de transformación y comercialización

a un producto que lo necesita en un producto como este cuyo fundamento es la naturaleza la ruralidad y la artesanía que es como el vino de rioja alavesa

con alguna o algunas de mayor volumen las cuales

si no es así el fracaso a medio plazo está garantizado otra cosa es

que las empresas que dotan de volumen a un sector actúen con la suficiente profesionalidad honestidad y prudencia como para no poner en riesgo exportaciones proveedoras de materia prima en este plan estratégico elaborado conjuntamente

les puedo garantizar que por ningún lado aparece una acción tendente a subvencionar

tampoco aparece la solicitud de un cambio de actitud de lo hasta ahora hecho todo lo contrario de reforzamiento de lo que se viene haciendo de una aceleración

sin cuestionar que el mismo esté estructurado básicamente alrededor de pequeños y medianos proyectos como hasta ahora por un lado

les puedo garantizar que el gobierno ha trabajado con intensidad hasta lograr un acuerdo que permita a los proveedores del impagador a proveer a clientes de pago seguro y eso

pueden seguir trabajando con la garantía de cobrar ahora hay que trabajar para reflotar la empresa deudora y lograr reembolsar en el menor en el menor plazo posible la deuda completa y por otro lado

no era otra que pedir al gobierno que intensifique los trabajos para encontrar fórmulas que permitan a los pastores un pronto cobro de la deuda pero sin que ello nos

que no es otra que diseñar y ejecutar una estrategia global del sector ovino de leche en euskadi razón por la que la transacción que nosotros hemos presentábamos en la enmienda

una abordamiento de ayudas orientadas a las necesidades del sector para lograr que este avance seguro por la senda del crecimiento sostenido en ningún caso

porque no se sabe hacia donde salvo que quieran ir hacia donde ahora y desde hace tiempo se va yendo

presidenta me dice el señor tellería que la propuesta inicial nuestra de creación de un fondo no es viable sí es viable no sería la primera vez que hace

dudas serias dudas es si es legal dar dinero a una empresa que debe a unos proveedores

sin información y luego esa empresa en vez de pagar hacer

del dinero pagar paga a algunos

a no sabemos qué opaco

opaca y que no ha conseguido el objetivo que parecía que estaba buscando el gobierno desde luego la prueba está en que hay muchos ganaderos que no han

hasta donde yo conozco la única pega que ponía el señor tellería para firmar esta enmienda

y lo que usted ve como algo negativo para mí es un piropo al gobierno reconocerle que tiene alguna política

que cambie la política es porque creemos que tiene alguna pues mire este gobierno no tiene ninguna

cero de las políticas que tiene este gobierno en el sector ganadero y en el sector primario

y solo hay que ir a los presupuestos qué han hecho ustedes en los presupuestos

cero y de las que había las han recortado entonces que dice que orientemos qué cómo decía qué orientemos el rumbo de esas políticas

yo lo que creo señor tellería que lo que tenemos que hacer es propiciar que se fortalezca

para qué para que tengan más fuerza ante de las negociaciones

están condenadas a entenderse pero con más fortaleza

y ustedes no han aplicado la ley de mejora

para impulsar que se creen asociaciones que se

etcétera etcétera etcétera por lo tanto creo que lo que le décimos en esta iniciativa al gobierno es lo que no hace

igual en estos dos años se pone las pilas y empieza a hacer algo

sí señor tellería las circunstancias del sector han cambiado pero han cambiado a peor

importante no anclarnos en el pasado mejorar en la defensa del sector creemos que es necesario nuestro grupo el partido socialista trabajamos pensando en solucionar y solventar

y en la cual peligra su situación señor tellería hay que trabajar y mirar por el futuro estas decisiones que adoptamos son necesarias porque las pide y las demanda el sector nuestro grupo

y las circunstancias por las que atraviesa este sector con todos sus problemas preocupaciones y pensando en su mejor futuro

en el sector ovino de nuestra comunidad nos parece que son importantes trabajar con el sector primario para conseguir generar actividad de mayor valor añadido de forma que existan sensibilización por el consumo de productos

por su sostenibilidad e implicación en la gestión del territorio se debe evaluar anualmente el plan de ayudas del sector agroganadero para responder adecuadamente a sus necesidades se apoyarán y concederán más ayudas

y a la integración de la mujer la profesión del pastor requiere una alta disponibilidad en el trabajo y se caracteriza por unas duras condiciones

que en cierto modo explica la extensión que el problema del relevo generacional presenta dentro del sector el papel de la mujer en el sector ovino las mujeres son las que en mayor medida sufren la negativa

la posibilidad de que las mujeres sucedan a sus padres en la explotación constituye un proceso ciertamente complejo y singular

y esto genera una identidad de mujer rural capaz de convertir en agricultura profesional por decisión propia la formación

los ganaderos de ovino mi grupo el partido socialista solicitamos mejor y mayor formación a las personas que tienen dedicación

gestión y comercialización de la ganadería y en concreto con el sector ovino debemos colaborar en la formación deben las asociaciones y entidades de desarrollo e investigación profesionalizadas de producción transformación

deben sentirse apoyadas social y económicamente el sector primario por este gobierno que debe velar con mayor compromiso en proteger

es necesario que se sirva de la adquisición de valores en el sistema del manejo de las razas locales respetuoso con las personas

gestionando el terreno a través de la utilización de los pastos para el mejor desarrollo y forma adecuada de dinamizar el sector ovino

pueda contar con la coordinación entre los ayuntamientos diputaciones forales y el gobierno vasco entre todos deben trabajar aplicando

para potenciar los escenarios existentes y también buscar nuevas actividades es algo fundamental para el desarrollo de nuestra comunidad

sobre todo la población más joven al ofrecer nuevas actividades que eviten el envejecimiento de la población instituciones que he nombrado y que deben sentir la importancia y trabajar por el futuro del sector agroganadero

los intereses de los ganaderos en la aplicación de la política agraria común muchas gracias eskerrik asko

cuando esa empresa que por cierto no es una gran empresa

bastante pequeña sugirió y solicitó

es cierto y sigue habiendo más producción de leche que transformadores en queso

tenga comportamientos desleales ilegales erróneos pues eso es un problema de ese empresario y tendrá que ser la administración la que intente ponerle orden pero no la propia existencia de la empresa como tal

pero es que con usted ya renunció porque su visión del sector y la mía es que son radicalmente diferentes

pero lo que usted y yo pensamos que es el sector agrario conclusión señores parlamentarios somos discrepantes radicales lo que él piensa y lo que yo pienso

vale pues a partir de ahí con usted renunció a seguir debatiendo qué es el sector ahora

sí me sorprende que por ejemplo la señora fresno del partido socialista diga que hay que cambiar cuando ellos en el gobierno hasta hace tres días

que hoy está diciendo que cambien que son los mismos decretos que teníamos nosotros y que son los que habilitan fundamentalmente los pequeños y los medianos los mismos decretos de ayudas la misma incentivación es más les invito a que vean del dos mil diez al dos mil catorce las ayudas que se dieron en la que sería el gobierno vasco que las lean si ven alguna

he cogido los cinco últimos puedo ir más allá la más grande es aldanondo que es una pyme

claro que se le han dado siete millónes de euros como usted ha dicho sabe cuanto puso aldanondo y que conste que no

veintinueve millónes de euros sabe una ayuda que se le dio en el año dos mil once a una cooperativa que ustedes citan en la transacción un proyecto de cooperación

cero patatero ese tipo de cosas ocurren

se llevaun montón de años haciendo de una manera las cosas y en estos momentos hay un plan estratégico recién terminado con el sector

señora lópez de ocariz jamás el gobierno vasco le ha dado dinero a aldanondo para pagar las deudas ni bajo manga y si usted dice una acusación como lo que ha hecho tan fuerte

tendrá que demostrarlo porque es muy fuerte sí hay unos confirming de bancos bancos que dan unos confirming no con dinero del gobierno eso no tiene que ver

espero que en algún momento niegue lo que ha dicho porque no es verdad el gobierno vasco no ha dado un duro a aldanondo para pagar a los pastores todo lo contrario

respecto a la transacción el uno y el cinco vamos a votarlos afirmativamente más que nada porque son la enmienda que nosotros presentamos aunque ustedes la han deteriorado literariamente es decir la nuestra era mucho más

la estética suele ser a veces importante respecto a la dos y la tres

vamos a decir que no creo que es la dos porque o la que

no vamos a cambiar las políticas porque ustedes cuando están diciendo que apoyemos a los pequeños y a los medianos es lo que hace esta política

léase el lehiatu y verá lo que está apoyando el lehiatu entonces no vamos a decir que no y vamos a abstener en las otras dos básicamente porque es lo que se está haciendo y además jamás he visto una enmienda de transacción

de cooperativas y de marcas podían haber utilizado otras yo si tuviera una quesería de idiazabal y viera que no sale mi nombre de quesería en esta

entonces no nos gusta en cualquier caso nos vamos a abstener porque la idea que rezuma nos parece

fundamentalmente el diferencial con el señor lazarobaster

es que sí es una cuestión de tamaño lo que usted cree enorme a mí me parece pequeño muchas gracias eskerrik asko tellería jauna

hay algún problema para que se vote por puntos no vale bozketa puntuka egingo dugu

ados jarri el partido socialista señora fresno

para que se oiga se puede votar por puntos

dejarían votar por puntos esto y si alguien diga que no que diga que no eskerrik asko luisja tellería hori da galdetu dudana

se oye sí ninguno de los tres grupos que firmamos la enmienda de transacción queremos votar por puntos

alguien quiere enredar no queremos votar por puntos lo entienden

sí presidenta no tenemos ningún problema de hacerlo de las dos maneras no hay problema

quiero decir que no tenemos ningún problema de hacerlo por puntos nada más hori da hasieratik esan duzuna eso es ados de acuerdo